baztertuak dauden taldeengan el dictamen formulado por la comisión de educación en relación con

señorías que tengo el honor de presentar para su debate hoy aquí consta de una exposición de motivos cincuenta y dos artículos tres disposiciones adicionales uno transitoria y tres finales

entró por primera vez en esta cámara como proyecto de ley durante la pasada legislatura y

en esta legislatura siendo valorada con el criterio positivo del gobierno el valor de la educación del aprendizaje como instrumento de desarrollo personal

y también como principal factor económico es el fundamento de esta ley porque la prosperidad

ha permitido el aprovechamiento eficiente de los recursos materiales e inmateriales disponibles

seguramente la importancia de circunstancias políticas relevantes podemos afirmar que la riqueza material pocas veces ha sido el factor más relevante para el desarrollo de los países o regiones en las que esta se encuentra y ejemplos tenemos muchísimos en la historia

explotado por los banqueros holandeses y si queremos ejemplos contemporáneos no tenemos más que mirar a áfrica con innumerables riquezas materiales y sin progreso y al otro lado de la balanza japón

ni aluminio ni café ni hierro solo tiene terremotos montañas fukushima pero eso sí ciento veinticinco millónes de ciudadanos altamente cualificados de ahí la importancia y la

con la que el grupo socialista subraya la necesidad de conocimiento la necesidad de educación y la investigación para mejorar la competencia y la

más conocimiento es igual a más empleo a mas competitividad a más desarrollo económico y social y necesitamos sin duda el talento de todos para modernizar el país y este es justamente el primer objetivo de la ley del aprendizaje a lo largo de la vida el reconocer el derecho de todos

a tener educación a aprender como factor de transformación decisivo para convertirnos en esa sociedad y en esa economía avanzadas del conocimiento que es la que impulsa europa con esta ley por tanto

a la europa del conocimiento confirmamos la estrategia de lisboa

a partir de esta ley señorías es la demanda

la oferta y este es un cambio de paradigma importante la que lidera el proceso de aprendizaje requiere esto un cambio de registro y un gran esfuerzo de coordinación entre las distintas administraciones públicas para fortalecer la oferta

valdrá se reconocerá la formación inicial la de la escuela también reconoceremos la experiencia laboral toda esa

toda ella será reconocida por el llamado dispositivo de reconocimiento de la competencia lo cual es una cosa importante es un cambio cultural

en las competencias básicas para garantizar la inserción social y laboral de las personas más desfavorecidas y para ello flexibilizamos todos los itinerarios formativos y facilitamos el acceso a la formación a través de las nuevas tecnologías de comunicación

por lo tanto como segundo objetivo de la ley desarrollamos todo un sistema y regulamos un sistema integrado de formación profesional que no solo va a atender a la formación

continua y ocupacional como la llamábamos antes regulamos por lo tanto

esa formación profesional integrada cómo son los centros integrados y qué requisitos deberían cumplir el tercer objetivo es el desarrollo de un sistema de orientación hay muchas personas que no saben todavía dónde acudir qué hacer este es un objetivo que va claramente destinado al rescate de nuestros jóvenes que están en situación desfavorecida que se han desenganchado del sistema que han perdido el camino para su inserción laboral

de formación está sobre todo sujeto también a la formación a distancia creamos el instituto vasco de educación a distancia

damos una gran importancia señorías a esta orientación además la ley prevé la creación del consejo vasco de aprendizaje a lo largo de la vida como órgano

y de coordinación de las distintas iniciativas en este campo lo que viene a ser el cuarto objetivo de la ley un órgano este que implica a todos los ámbitos institucionales gobierno vasco diputaciones y ayuntamientos en un trabajo conjunto para impulsar ese aprendizaje a lo largo de la vida con esta ley señorías queremos ayudar a dar respuesta

como es la del empleo es pues una herramienta concreta para poder trabajar en ese entendimiento necesario sobre políticas de empleo

mejorando la empleabilidad de las personas mejoraremos sus capacidades y sus oportunidades de empleo agradezco finalmente en nombre del grupo socialista

los acuerdos alcanzados entre todos los grupos de esta cámara yo creo que hemos alcanzado un buen resultado integrando las perspectivas plurales de todas las formaciones políticas que se encuentran en este hemiciclo señorías con esta ley hacemos una aportación muy importante a la europa del conocimiento y cumplimos hacemos verdad aquel proverbio

para diez plantar árboles y para toda la vida educar y formar

sí el grupo socialista ha reservado tres votos particulares en esta ley

dos hacen referencia a la definición de unidad de competencia señorías es claro que unidad de competencia

unidad de competencia es la unidad divisible menor en la que puede configurarse

pero la unidad de competencia no se refiere no se hace atribución a la unidad de competencia cuando se habla ni de títulos ni de

por tanto lo que proponemos en el artículo dos como ustedes ven proponemos la supresión de la definición de unidad o elemento de competencia que se recoge en subpunto diez y que lleva el siguiente literal unidad

de los módulos profesionales o formativos de los títulos de formación profesional

o de los créditos de enseñanza universitaria en el marco del sistema europeo de transferencia de créditos consideramos señorías que esto es una definición equivocada es erróneo hablar de unidades de competencia en relación a títulos y sobre todo en relación a créditos pero peor todavía nos lo pone este es el artículo dos creo que es el artículo quince

cometemos dos errores en vez de uno y es mandatar en primer lugar a la universidad a que trabaje con unidades de competencia

y en segundo lugar decirle que también tiene que organizar sus créditos en unidades de competencia los créditos señorías como todo el mundo sabe son

la unidad mínima en la que se trabaja en la universidad y además están sujetos a toda la

por lo tanto nos parece que técnicamente el artículo quince se equivoca también ahí lo que proponíamos era suprimir la última frase simplemente

cuando habla de universidades y por último tenemos el tercer voto particular que hace referencia al marco vasco de cualificaciones profesionales

están tremendamente unificadas tremendamente conjuntadas porque claro no podemos trabajar cualificando a una persona de una manera propia para que a partir

tanto esto es así que hasta incluso el catálogo nacional de cualificaciones profesionales

que las tipifica en seiscientos y pico cualificaciones profesionales se queda pequeño también y en este momento se está trabajando en lo que es el marco

de cualificaciones profesionales por tanto marco vasco de cualificaciones profesionales no nos parece eficiente nos parece una tarea

acorde a la legislación vigente esos son nuestros tres votos particulares como ven ustedes tienen muchísima parte técnica y desde luego
yo creo que merecen el respaldo de esta cámara con el fin de mejorar la legislación que tenemos entre manos nada más y muchas gracias eskerrik asko

porque se refiere a las unidades de competencia guri iruditzen zaigu

en el artículo dos señora celaá no se tocan títulos

de los conocimientos adquiridos aunque no se haya finalizado la totalidad del aprendizaje

según parámetros perfectamente definidos y en el marco del sistema europeo de transferencias de créditos

queda claro el motivo de por qué estamos en contra el artículo cuarenta y siete hombre si elaboramos una ley como la que nos ocupa

de nuestro propio modelo social y económico debemos dotarnos de instrumentos que nos permitan actuar conforme a nuestro propio modelo y eso es lo que estamos haciendo precisamente

simplemente para subrayar que el término unidad de competencia

es una cuestión técnica no podemos hablar de unidades de competencia refiriéndonos ni a los títulos ni a los créditos

de los dos votos particulares al artículo dos y al artículo quince y esto es técnico

la afirmación de lisboa dos mil de

dos mil veinte nada tiene que ver las unidades de competencia se relacionan exclusivamente con las administraciones laborales y con los certificados de profesionalidad

no con los créditos por tanto es una cuestión técnica técnica técnica en relación al marco vasco de cualificaciones

nosotros afirmamos como lo venimos haciendo siempre nuestras propias potestades y competencias tanto es así que nos queremos que nos estropeen la educación tampoco

ni tantas cosas pero eso no tiene nada que ver con que nosotros no queremos generar

solo cualificaciones que no vayan a valer que no vayan a ser reconocidas en el momento en que la persona cambie de comunidad o cambie de país

vasca reconocida en españa y en europa y eso quiere decir hoy por hoy atenerse al catálogo nacional de cualificaciones y probablemente

al catálogo europeo que está en marcha y completándose nada más señorías eskerrik asko

le plantearía una cierta contradicción a su propio gobierno todavía hace

en comisión el grado de gestión de emergencias que como usted bien sabe no es grado como tal

ustedes lo plantean y lo defienden y no es un grado por la duración como bien sabe

entonces por ejemplo no sé cómo lo encajaríamos por ejemplo luego

nos dice claro que se puede no aceptar en otros sitios pues bueno pues aquí tiene el propio ejemplo que le acabo de poner con respecto a lo que nos está diciendo claro lo que tratamos es de hacer una transposición fiel de la legislación básica para qué nos plantean ustedes una proposición de ley como la que nos han planteado o esta u otras incluso

si apoyamos directamente y tal como está la legislación básica estamos respondiendo a un modelo que no es el nuestro sino el modelo que establece la legislación básica

bastante inferior al que nosotros tenemos y defendemos por lo tanto una de dos o una cosa o la otra las dos a la vez no puede ser usted nos puede decir

y luego no apliquen la legislación básica que viene del estado

o sea la ley municipal y esas ya son leyes estructurales palabras mayores

una serie de iniciativas tendrán que pensarse seriamente lo que nos están planteando eskerrik asko

dauka hitza una pena señor agirrezabala que a usted

el avance con respecto a lo que teníamos suficiente digo porque ha anunciado una abstención creo recordar y eso

me apena porque sobre todo el noventa por ciento diría yo de las propuestas que usted trajo a comisión fueron debatidas a fondo e incorporadas al texto de una manera o de otra igual más del noventa por ciento

están tan en el texto que si hablamos de persona como centro del universo de la ley

ni siquiera hemos reflexionado suficientemente de lo que significa porque poner la demanda de la persona en vez de la oferta en el centro y fundamento de la ley significa un cambio de paradigma tal que desde luego desde la cuna hasta la tumba cualquier persona demandante

tiene el derecho a ser atendida y esto está en el corazón de la ley por tanto señorías que la persona está ahí

tiene poca duda pero dice usted más dice usted que el euskera no ha sido suficientemente reconocido mire usted y yo creo que sí yo creo que el euskera

sino por toda la legislación vigente en el país vasco tiene el euskera puesto de honor y en todos los centros educativos se le da

por lo tanto es más la ley ha introducido todo lo que significa la regulación y ha llevado la regulación de habe etcétera para las personas adultas por tanto esto también tiene poca duda

las principales herramientas para llevar a cabo esta ley tienen reconocida la autonomía por ley por ley por tanto también tienen autonomía suficiente para poderla llevar a cabo y luego con respecto al ámbito

al ámbito legal ese es su ámbito de actuación si usted me habla de euskal herria en los términos del estatuto de autonomía

ni un solo problema porque esta ley está dentro del ámbito del estatuto de autonomía

no tenemos otro de momento no no tenemos otro por tanto esta ley se ajusta a la legislación vigente al estatuto

en el ámbito del estatuto de autonomía ni un solo problema si usted me habla de que esta ley

va también a ser competente sobre navarra

iparralde pues yo le digo que no por tanto seamos serios vamos a saber qué estamos diciendo si estamos hablando de euskal herria en los términos del estatuto de autonomía adelante

razón alguna para que usted se abstenga si usted me permite esta opinión más del noventa y tantos por ciento de sus enmiendas han sido incorporadas a la ley y el resto
están absolutamente subsumidas con claridad gracias eskerrik asko

zuk gordetako zuzenketa batzuekin en las relacionadas con conceptos

se optó en la ponencia a que en algunos casos y en función del contenido de la norma se utilizase uno de dichos conceptos en otros casos otro y en algunos casos ambos conceptos

el texto muy grande con respecto al ámbito competencial

los contenidos incluso su constitucionalidad no constitucionalidad etcétera el ámbito que tenemos es el que tenemos en el ámbito espacial al menos

es el de la comunidad autónoma del país vasco y tampoco hay ninguna otra posibilidad ahora mismo no lo demás sería ya condenar de saque

lo que estamos diciendo es que la forma de llevar la autonomía a la práctica tiene que estar consensuada con los agentes educativos

y eso es lo que está en la enmienda en una de las enmiendas si lo tienen muy sencillo

y también por ideología porque nos parece que es fundamental que los centros tengan autonomía ahora bien ahora bien nos parece fundamental que la forma de llevar a la práctica la autonomía tiene que pasar con un acuerdo con los agentes educativos y con los agentes sociales

porque nos parece fundamental y básico eta azkenik

zuk esan duzuna si el euskera tiene un puesto de honor en esta ley

en este momento tiene aukera tiene la oportunidad de demostrarlo votando nuestro articulado besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna

isiltasuna respondemos a una concepción evolucionada de la educación

un documento una ley de primer orden porque puede abrir

laborales formativos e intelectuales pero que en cualquier caso regula y pone en valor la necesidad de responder desde los poderes públicos

democrática educar y formar y hacerlo además en cualquier momento de la vida resulta necesario adaptar los sistemas educativos y de aprendizaje

viven y organizan su existencia y por ello debemos adaptar nuestro sistema pensando y legislando más allá por los modos tradicionales de planificar la vida

hoy incorporamos en nuestra estrategia formativa el objetivo de la unión europea de contribuir con el aprendizaje permanente al desarrollo de la comunidad como sociedad del conocimiento avanzada con un crecimiento económico sostenible más y mejores puestos de trabajo y sobre todo también una mayor cohesión social y ahí enlazan

esta ley aprendizaje permanente e innovación tecnológica

y ciudadanía activa y con esta ley en definitiva señorías se dota a los ciudadanos de las oportunidades para adaptarse también a las demandas que impone

y la transformación económica muchas gracias eskerrik asko semper jauna gai zerrendako

defensa del dictamen

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos se tomó en consideración en este parlamento la proposición

por el partido nacionalista vasco ezker batua y bildu y que tenía como objetivo fundamental prohibir

de exploración y explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking en principio nosotros compartíamos el objetivo de la iniciativa aunque finalmente

gobierno vasco nos abstuvimos en su toma en consideración el gobierno vasco mostraba su criterio favorable a la toma en consideración pero nos recordaba

genéricas de usos y actividades amparadas en la protección del medio ambiente finalmente

el grupo de los populares vascos y los socialistas vascos votaron en contra y nosotros nos abstuvimos

actividades prospectivas o extractivas y por otro lado aumentar el ámbito protector de la ley

a partir de ahí durante los trabajos de la ponencia se conformó un amplio consenso entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista y el partido popular eh bildu no participó y a nosotros no se nos aceptó ninguna enmienda

en su momento por ello por los argumentos escuchados al resto de grupos parlamentarios por los argumentos escuchados también a los grupos que defendieron la iniciativa original tanto el partido nacionalista por un lado como bildu y ezker batua por otro me refiero a los grupos de las juntas generales llegamos a la conclusión de que debíamos apoyar el informe de la ponencia cosa que hicimos en comisión celebrada a comienzos del mes creo que aunque el texto definitivo no recoge la prohibición taxativa del empleo de la técnica del fracking en espacios naturales la condiciona suficientemente y en todo caso es

razón por la cual finalmente hemos votado a favor nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den

gracias señora presidenta señorías buenos días efectivamente esta cámara tomó en consideración una proposición de ley

en la que el grupo popular votó en contra en juntas generales de álava y también votó en contra en esta cámara en la toma en consideración porque como bien decía el gobierno

sobre la ilegalidad del establecimiento de prohibiciones genéricas de usos y actividades amparadas en la protección del medio ambiente debiendo ser los concretos instrumentos y de uso y gestión de cada espacio protegido los que decidan en última instancia la oportunidad o no de que dentro de sus límites se den actividades extractivas

a pesar de haber votado en contra en esta cámara de la toma en consideración porque nos parecía un mal precedente tomar en consideración propuestas que no se ajustan a la jurisprudencia

somos demócratas por si alguien no lo tiene claro presentamos

con el ánimo de modificar la ley de acuerdo a los dicho por el tribunal constitucional y participamos en la ponencia

gran parte de nuestras enmiendas y otras fueron transadas con esta modificación queda meridianamente claro que

de espacios naturales protegidos y sus zonas de afección serán los propios instrumentos de planificación y gestión de cada espacio los que determinen si una determinada actividad extractiva o instalación es compatible o incompatible con los valores ambientales

y que en caso de que se declaren compatibles será necesaria la preceptiva evaluación de impacto ambiental individualizada incluirá todos los trabajos necesarios para la reposición a la situación anterior y la recuperación de los valores ambientales preexistentes

esenciales para clarificar la gestión en aquellas zonas donde se solapan

proponiendo que las normas reguladoras y los mecanismos de gestión se coordinen y unifiquen en un solo documento todas estas medidas también se especifican las modificaciones que hemos

que son las diputaciones forales quienes elaboran los planes de gestión para las zonas especiales de conservación

y zonas de especial protección para las aves zonas

aspecto este que viene generando polémicas como ya hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones en esta cámara y que nos parece que

por lo tanto el grupo popular comparte plenamente las modificaciones

y por eso hemos votado a favor nada más muchas gracias

hoy termina un proceso que empezó la legislatura pasada como ya se ha dicho aquí

hemos aprobado una modificación de ley que corrige un error anterior y que completa el texto legal para mejorarlo quisimos prohibir cualquier explotación de áridos en zonas protegidas cometimos un error

jurídicas la decisión inicial la tomamos los políticos la consecuencia de la misma la pagan los ciudadanos vascos con sus impuestos y por añadidura la protección que buscábamos y buscamos se convirtió en inútil

a quienes quisimos poner límites podían continuar tranquilamente actuando como lo estaban haciendo hasta el momento este es un tema que viene desde la legislatura pasada como hemos dicho es un tema

y en opinión del grupo socialistas vascos muy utilizado para confundir a la ciudadanía lo que hoy pretendían quienes han votado en contra no se incluyó en dicha propuesta inicial la prohibición del fracking nunca apareció

se han excusado para votar en contra de la propuesta el grupo socialista se opuso expresamente a la toma en consideración de la iniciativa traída aquí por la juntas generales de álava y esto puede parecer contradictorio

hemos acabado respaldándolo y resulta que esta aparente contradicción es un ejercicio de coherencia porque en febrero ya advertimos aquí de

que se justificaba en unos motivos que no iba a entrar en el trámite final

el dictamen ha recogido lo que algunos advertimos allá por el mes de febrero

haciendo creer que esto iba a resolver las preocupaciones legítimas en torno al fracking serán otros quienes tengan que dar explicaciones por eso hoy con el dictamen aprobado cerramos las puertas a las actividades económicas que dañan de forma irreparable nuestras zonas protegidas

para lucrarse sin preocuparse por el impacto que generan en las áreas que hemos decidido proteger y cerramos las puertas a quienes no asumen la totalidad de las garantías adicionales en materia medioambiental que hemos incluido en esta ley

abrimos las puertas al debate sobre la extracción de hidrocarburos en euskadi un debate en esta cámara que no ha sido posible hasta ahora porque algunos se obcecaron en vender lo invendible un debate en el que podríamos haber avanzado ya

a partir de la propuesta que tenemos en las manos llegado con las miles de firmas de ciudadanos si no hubiera sido porque algunos se empañaron

las abrimos a debatir las condiciones que decidamos poner a cualquier intención de explotación de hidrocarburos porque el grupo socialista ni huyó ni huye

cerradas las puertas a los abusos en la extracción de áridos es importante que comencemos a abrir las puertas al debate que estos ciudadanos traían a la cámara buscando el equilibrio entre el voluntarismo y la responsabilidad sin dogmas sin apriorismos y sobre todo trabajando en las cámaras para que las leyes que se traigan acaben recogiendo los contenidos legales que aquí se necesitan el fracking es un tema pendiente es un debate que se debatirá en esta cámara si la iniciativa legislativa popular se constituye en ponencia y todos tendríamos que poner blanco sobre negro sobre lo que pensamos

no era el objetivo que tenía el objetivo estaba claro y cuando alguien trae este debate a la cámara sabe que las reglas del juego son aceptar lo que la cámara democráticamente decide

por lo tanto como ha dicho la señora lópez de ocariz es de demócratas respetar y asumir lo que la cámara ha decidido nada más muchas gracias eskerrik asko

en ambos casos impone líneas de pensamiento o para el bienestar socio económico o para el bienestar socio natural algunos les llaman ecocapitalismo y ecosocialismo pero

centro de toma de decisiones sobre el resto del mundo vivo hecho el introito

hemos votado que sí porque atendiendo a la expresa solicitud de las juntas generales de araba

se prohíben igual que el resto de usos incompatibles con los valores ambientales que se pretendan proteger gasaren erauzketa eta beste

teknika horiek kaltegarriak izanda ere no se puede modificar una ley

aquí tienen un texto que permitirá prohibirlas todas votamos que sí porque deriva la decisión

de cada espacio protegido es decir al gobierno y a las diputaciones forales

órganos que consolidó la ley de conservación de la naturaleza y que exigen la participación de ayuntamientos concejos grupos sociales agricultores ecologistas resultando un modo de hacer más democrático el que sean los propios habitantes de la zona los que dispongan en función de los criterios generales de la ley

votamos que sí porque la fórmula propuesta protege los espacios de una manera más completa que la propuesta original con similar contundencia con mayor seguridad jurídica y con una superior participación social y democrática beste aldetik alde bozkatu dugu

eta patronatuak la ley empezó a aplicarse de un modo impostor al tiempo de llenarse de despotismo ilustrado tan propio de los ecólogos políticos

la técnica y alguna ciencia enseñaban e imponían al mundo rural al que por cierto tratan de irresponsable cómo ha de conservar el espacio su espacio vital espacio que por cierto si alguna vez nos fijamos en él para preservarlo lo fue

esta modificación restaura el esquema competencial repone la necesidad de consenso entre protectores y protegidos entre comillas

en definitiva votamos que sí porque legislar sobre naturaleza

por un lado de la necesidad del ser humano que tiene para sostener su sociedad y reclamar su propio espacio en el medio natural y por el otro la exigencia de abordarlo dejando a la naturaleza su espacio y su tiempo para que restaure y se reequilibre por cierto

nuestro sí es un no al modelo de ecología política o de materialismo dialéctico trasladado a la naturaleza o gestionar la biodiversidad a base de planes quinquenales más que proteger la naturaleza la conservan

obviando la dinámica autónoma del propio medio natural es un sí porque es un no a instalarse en el despotismo ilustrado

es el no os preocupéis aunque no lo entendáis esto es bueno para el país y para vosotros es derivar la decisión a una didáctica a largo plazo es digamos

si prefieren en el atezateismo nuestro sí

y a quien cuando no tiene mayoría sin ideas ni imaginación

eso sí arrogándose la exclusiva del ecologismo el profesor margalef

reflexionó pensar que el hombre forma parte de la naturaleza

lo importante es mantener una actitud abierta procurando esquivar

porque tienden a ver al hombre como algo muy a parte de la naturaleza con el destino de ser su dueño

konklusioa amaiera conclusión nuestro problema es aprender a ser una especie más

cuando es natural la naturaleza al conservar dos trozos de monte y pasto entre legutio y otxandio o al modificarlos haciendo dos enormes agujeros

pienso que quizás la naturaleza pueda ser igual de natural en ambos casos eskerrik asko eskerrik asko telleria jauna gai zerrendako hirugarren puntua

con qué decisión nos encontraremos dentro de unos días en el boe

en sus ataques a la salud de las personas y que nos volveremos a enterar una mañana al leer el boletín porque

así es como ha sucedido en esta ocasión un día después

y sin aludir a ninguna medida el boe publicó una orden dictada una semana antes añadiendo a la lista de dañificados por el gobierno de rajoy ahora a quienes padecen cáncer hepatitis soriasis

es decir enfermedades graves y crónicas que en lugar de ser tratadas mediante un ingreso hospitalario se requiere control hospitalario pero el tratamiento lo hacen en sus hogares esta medida se ha tomado con premeditación y alevosía es un nuevo torpedo contra el derecho de la protección de la salud del conjunto de los ciudadanos

desfavorecidos que son quienes padecen estas enfermedades tan graves como las citadas porque además de que es una tropelía sanitaria es ineficaz

sabemos que el copago farmacéutico está provocando ya que algunas personas no recojan en las farmacias los medicamentos que les han recetado los médicos

ahora estamos hablando de fármacos que el paciente se lleva puesto desde el hospital

por eso esta última medida del gobierno de rajoy demuestra que tiene un único fin recaudatorio al igual que el otro copago pretende solo

que hay que reducir la factura de la farmacia pero hay que hacerlo de otra manera existen otros recursos para reducir la factura de la farmacia

o dosis adecuadas a cada tratamiento o gestionando de forma amplia la adquisición de fármacos o sacando a subasta la compra de lo mismo pero sobre todo

del médico que es quien prescribe sin abandonarlo a los intereses de los laboratorios farmacéuticos que son los que realizan voluntariamente la tarea de informar de sus novedades y de las bondades de sus productos

hay que fomentar la necesaria coordinación y comunicación entre los médicos prescriptores de medicamentos y la administración para prescribir únicamente los fármacos que hayan demostrado su eficacia y eficiencia que resuelven el problema que se pretende resolver y que resultan costes sostenibles todas estas medidas sí contribuyen al sostenimiento de un sistema

y sostenible que es de lo que se trata con decisiones centradas en el paciente y no contra el paciente como son estas medidas de implantación de copagos como decíamos esa es la vía del ahorro no que el ciudadano pague dos veces por un servicio que ya ha abordado con sus impuestos

están excluidos del circuito de las farmacias por eso al gobierno se le habían quedado fuera del copago que comenzó hace algo más de una año y que en euskadi se está aplicando desde el uno de junio son fármacos

ni siquiera resulta rentable para las boticas se distribuyen por los hospitales porque los enfermos tienen tratamiento hospitalario como décimos aunque no estén ingresados

permiten reducir ya de por sí el coste de los medicamentos en torno a un veinte o veinticinco por ciento son menos caros

no vio a los enfermos no vio al colectivo de enfermos lo que vio es cómo exprimir aún más a los enfermos la ministra que ya se sentía orgullosa

que vía impuestos le habían llegado precisamente para sostener los servicios sanitarios pues ya se podía presentar orgullosa ante el responsable de hacienda y explicar que había cumplido su parte del tajo a los servicios esenciales a los ciudadanos pero decidió añadir una muesca más

la campeona de la lucha contra el déficit pone en bandeja esta nueva oferta ante los altares de quienes intentan segar el estado de bienestar pero esta vez y menos mal ha habido una reacción importante incluso los suyos de le han revuelto

empezado a aplicarse una medida que en cualquier caso está vigente desde el uno de octubre

hubiera sido uno de los grupos que hubiera presentado hoy aquí una iniciativa en el mismo sentido quisiéramos que

al igual que lo han hecho compañeros suyos de otras comunidades autónomas

en nombre de los vascos y representarán a quienes les han votado y al resto de ciudadanos

con que se sumen a la petición que hoy traemos otros grupos aquí y del gobierno vasco

que además de ejercer cuantas acciones sean precisas para impedir que esta medida se aplique en el ámbito de su competencia que es euskadi incluyan en su anunciada regulación de compensaciones por copago una previsión para este y otros casos con los que nos pueda sorprender el gobierno de españa

para poner pie en pared contra los recortes sanitarios que nos han venido impuestos los argumentos ofrecidos por los socialistas son conocidos y además compartidos por la mayoría de los ciudadanos

esas en las que los vascos se oponen a esos recortes e indican que es preferible un mayor esfuerzo fiscal

desmantelamiento de nuestros servicios con los argumentos conocidos y compartidos traslado hoy aquí

más general sobre esta sucesión de tasajos a las prestaciones sociales específicamente las sanitarias a principio de año apareció en la prensa una noticia que duró un día el recién nombrado ministro de finanzas japonés anunció a los ancianos

para que el estado no tenga que pagar su atención médica

y ocultando que tienen la cartera llena aseguró que se sentiría mal sabiendo que sus tratamientos se los tenía que pagar el estado se refirió despreciativamente a quienes necesitaban una alimentación asistida como

tratamientos largos de enfermedades complejas todo esto lo dijo

responsable de poner en orden las cuentas de su país y no parece que nadie se haya escandalizado

y el segundo y no demasiado lejos debe de ser vivir

y algunos ya plantean y verbalizan un plan renove de la población

pero hay quien sin verbalizarlo y sin declaraciones quiere permitir que esto ocurra con todos los impedimentos que se están poniendo

a una sanidad gratuita y universal con la excusa como en el caso japonés del orden económico tantos avances en la investigación científica contra el sida contra el cáncer contra la artrosis contra la hepatitis

contra tantas y tantas enfermedades crónicas largas y graves y todo ello además para dejarlo accesible solo a unos cuantos

por eso comenzaba preguntándome qué será lo próximo qué nos traerá

con la justificación del índole económico negativo la ministra hoy por hoy parece no tener ni reparos ni límites

estamos muy de acuerdo con algunas de las cuestiones planteadas o con la mayoría de las cuestiones planteadas y con muchos de los argumentos expuestos

y con las propuestas originales también de ambos grupos en todo caso nosotros presentamos una enmienda de totalidad con el objetivo de mejorar las propuestas

complementarlas nosotros proponíamos con esta enmienda de totalidad que presentamos que este parlamento

por ser una medida innecesaria y profundamente injusta como aquí ya se ha dicho y por ello

que efectivamente retire la resolución del día diez de septiembre

comparezca ante el parlamento durante el presente mes de octubre para explicar la incidencia que la resolución tendría en euskadi y para dar cuenta por razones obvias de transparencia de cuantas medidas y decisiones vaya a tomar en relación a este asunto estas dos propuestas han sido introducidas en la enmienda transaccional firmada entre el grupo nacionalistas vascos y los socialistas vascos

votaríamos y por eso pediríamos la votación por puntos de esa

las justificaciones de las iniciativas planteadas por ambos grupos creo que explican perfectamente el nuevo copago hospitalario decidido por el gobierno de españa un nuevo copago por el cual un gran número de medicamentos para el tratamientos de enfermedades graves o crónicas en pacientes no hospitalizados pasarán a estar sujetos

el gobierno de españa tal como se dice pretende que las personas que precisen de estos tratamientos abonen un diez por ciento del precio de los mismos con un máximo de cuatro coma veinte euros

el cáncer renal los tumores cerebrales y el cáncer de próstata también incluye tratamientos contra diferentes tipos de leucemias y linfomas y varios antivirales

hepatitis b y prevención de virus respiratorios en niños y otros fármacos para tratar otras muchas dolencias en nuestra opinión se trata

cruel una medida cruel e injusta tomada por el gobierno de españa una nueva medida cruel e injusta que ha recibido por cierto el rechazo

unánime de todos los partidos políticos de la oposición de las asociaciones de pacientes de los propios pacientes de los profesionales de la salud

y de la inmensa mayoría de los ciudadanos y también de la inmensa mayoría de los votantes del partido popular una medida por lo tanto disparatada arbitraria injusta e ineficaz un sablazo cruel injusto

una nueva barrera que dificultará el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población a los sectores más sensibles de la población con las consecuencias

más desigualdad más problemas económicos más dramas personales y familiares más tratamientos abortados menos salud más gastos para el propio sistema sanitario

mientras el gobierno de españa nos anuncia que estamos apunto de cuadrar las cuentas esta es la forma que tiene el gobierno de españa de cuadrar las cuentas cuadrar las cuentas mientras lamina el estado del bienestar y mientras lo que antes se podía llamar como una sanidad pública y universal primero vino la implantación del copago y la retirada

de más de cuatrocientos fármacos de la financiación pública el medicamentazo

sin olvidar las reformas laborales para facilitar el despido y acabar con los derechos de los trabajadores la congelación del sueldo de los funcionarios los recortes en becas y en dependencia

ahora el cobro del diez por ciento del precio de los medicamentos de dispensación hospitalaria no es en nuestra opinión que el gobierno vasco ataque a las comunidades autónomas o a sus competencias esto incluso podría ser lo de menos

ataca a los ciudadanos y a su salud el problema es que el gobierno de españa ataca a la dignidad de las personas tenemos una sanidad pública

pero tenemos una sanidad cada vez menos pública y menos universal como consecuencia de los injustos y crueles recortes impulsados por el gobierno de españa este

obviamente nos oponemos nos hemos opuesto a todos estos disparates

a este último disparate por el gobierno de españa de ahí nuestra enmienda de totalidad y de ahí que vayamos a pedir la votación por puntos de esa enmienda transaccional que

nuen bezala la aportación del usuario en farmacia como todos ustedes saben

para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones

neurri hauekin diseñar un sistema como decía la semana pasada más justo equitativo y solidario ya que se tienen en cuenta en este nuevo copago

y se protegen a los colectivos más vulnerables aquellos que más están sufriendo la crisis económica

y personas que carecen de recursos hay colectivos exentos que antes pagaban el cuarenta por ciento de las medicinas como son los parados de larga duración sin prestación

la participación del usuario en la farmacia hospitalaria se reguló en diciembre del dos mil doce por lo tanto no es algo nuevo señorías no es nueva y la resolución del ministerio de sanidad publicada el pasado

pretende asegurar que en todos los medicamentos que se dispensan en el hospital y en los que pueda haber aportación del usuario tengan aportación reducida

léanla bien o con atención esto significa en consecuencia que todos los medicamentos incluidos en la lista publicada tendrán una aportación del diez por ciento

se pone por lo tanto tope a los medicamentos más costosos se vendan donde se vendan en la farmacia hospitalaria

así si un medicamento cuesta veinte euros se pagará dos pero a la vez

pero también algunos de estos medicamentos costosos se dispensan en las farmacias de calle cuestan varios miles de euros el usuario hará una aportación de cuatro coma veinte euros por envase por ejemplo

el usuario aportará cero coma cinco por ciento de este precio

recogidos y de los que hablamos ya cuentan con aportación del usuario pues en algunas comunidades autónomas se dispensan en las oficinas de farmacia por lo tanto ya se paga por estos medicamentos en aquellas comunidades autónomas

otros medicamentos han estado en la oficina de farmacia hasta hace poco tiempo

y después se han trasladado a la farmacia hospitalaria parece por tanto razonable señorías que si los dos tipos de dispensación

que el paciente toma en su domicilio se rijan por los mismos criterios y los pacientes por lo tanto contribuyan en el mismo grado de equidad independientemente

y de la comunidad autónoma donde esté el ministerio con esta resolución quiere asegurar el mismo trato

a todos los ciudadanos con independencia de la comunidad autónoma donde vivan en cualquier caso estamos hablando de medicamentos de dispensación

y para tratamientos domiciliarios no de uso hospitalario por tanto es absolutamente falso que haya copago

como se ha tratado de vender por parte de algunos los pacientes hospitalizados no pagan por los medicamentos que reciben durante su estancia

y por otra parte están exentos de aportación los mismos colectivos que con el resto de fármacos pensiones más bajas rentas de integración social parados de larga duración ya dije el otro día que el nuevo sistema de aportación de farmacia ha permitido que en los últimos catorce meses se haya ahorrado la cantidad de dos mil trescientos millónes de euros

generado se han incorporado y financiado nuevos medicamentos más avanzados fármacos innovadores para enfermedades muy graves como el cáncer treinta y ocho nuevos medicamentos desde el dos mil doce entre ellos el afinitor para el cáncer de páncreas con un coste anual de treinta mil euros

el gobierno del partido popular una vez más ha cumplido con su responsabilidad de generar un marco normativo que garantice

de ellos la tercera parte en el ámbito hospitalario y que las recomendaciones de la unión europea han hecho hincapié en la necesidad de mejorar la eficiencia

farmacéutica hospitalaria como decía antes es por lo tanto absolutamente falso que se paguen por los medicamentos que

reciben los pacientes cuando están ingresados se ha garantizado por lo tanto el acceso de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad a los medicamentos más costosos que pasan a valer cuatro coma veinte euros como máximo cuando

del precio total eso es lo que se ha garantizado señorías con esta resolución y no tiene sentido que si un ciudadano tiene que pagar un medicamento en farmacia no haya disminución y si tiene que hacerlo en la farmacia hospitalaria si lo haya por poner un ejemplo muy claro el otro día explicaba el consejero el impacto económico en términos económicos de la aplicación de esta medida y efectivamente

respondió en el senado a propósito de una interpelación quiero recordar sobre esta cuestión es una medida de eficiencia

pero absolutamente necesaria para garantizar la equidad y la cohesión y garantizar las mismas condiciones de acceso a los medicamentos a todos los ciudadanos independientemente de dónde vivamos en qué comunidades autónomas residamos o independientemente de en qué farmacia hospitalaria adquiramos un medicamento en la farmacia de calle

del hospital fue durante la pasada legislatura cuando se autorizó la mayoría de los medicamentos incluidos en la resolución del diecinueve de septiembre con aportación del usuario medicamentos que se dispensaban en las oficinas de farmacia y con los que aportaban los pacientes

incluido los parados que ahora no tienen que pagar nada si entonces no les preocupaba como les preocupa ahora tanto esta cuestión señorías y señora roncal

haya donde gobiernan van a aplicar esta medida van a aplicar también aquí anunciaron que planteaban un decreto especifico

hubieran aplicado el decreto de abril de las nuevas medidas

que esta nueva resolución es más es que esto ha sido hablado con las comunidades autónomas en numerosas reuniones técnicas es que esto ha sido hablado con las comunidades autónomas en numerosas reuniones técnicas

y se trata de homogeneizar en la prestación farmacéutica para que no haya diferencias y acabar con la desigualdad

le digo lo mismo ustedes pues le pasa como lo del sueldo de los funcionarios

aplicando esta resolución ya le digo

durante su ingreso hospitalario ni tampoco como he dicho anteriormente por los que se les administran cuando están en el hospital

caos organizativo y un desbarajuste ochocientos mil personas

constaban como beneficiarios de otras cuando no le correspondía y este gobierno con todas estas reformas aparte de garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud con una deuda

pues ha tenido que hacer reformas y plantear medidas para garantizar

están generando ahorros que están posibilitando innovar y adquirir nuevos medicamentos por lo tanto señores menos demagogia y fijémonos en lo que estamos hablando

comunidades autónomas gobernadas por el partido socialista van a aplicar esta medida y que aquí en el país vasco finalmente se terminaba aplicando esta medida como pasó con el decreto aprobado

adierazpenetan que usted ha hecho una defensa de las bondades

pero evita posicionarse sobre si comparte que se tomen ese tipo de medidas como la que estamos debatiendo hoy referida a la resolución de forma unilateral invadiendo competencias de otras comunidades autónomas sin tratarse previamente en el

etcétera etcétera por lo que le he entendido con estas medidas

se ha saltado directamente la opinión que pueda tener el tribunal constitucional al respecto

porque yo lo valgo ha hablado del caos y desbarajuste que en el que está asumida

en la que se encontraba la del sistema nacional de salud con anterioridad y puede que sea cierto

sea no meta a todas las comunidades autónomas en el mismo saco porque eso no se corresponde con la realidad

para recentralizar y uniformizar el sistema nacional de salud de hecho

adoptando poco a poco beraz guk uste dugu kasu honetan